una iniciativa sobre la necesidad de modificar la legislación española que afecta a los contratos de prestamo hipotecario y los procedimientos de ejecución hipotecaria y para

contra los desahucios como es conocido el tribunal de justicia de la unión europea dictaminó por segunda vez que la ley hipotecaria española incluye cláusulas abusivas

la protección de los consumidores aunque la conocida como ley antidesahucios española preveía un abanico de casos en los que los firmantes de una hipoteca podían

y demostraban cláusulas abusivas durante el proceso la pérdida de la vivienda durante un procedimiento de ejecución era prácticamente inmediata

de dos mil trece que consideraba que los procedimientos de ejecución españoles dejaban desprotegido al consumidor el tribunal

diecisiete de julio dictó un fallo que vuelve a obligar a un cambio en una normativa que a día de hoy es

y por tanto perfectamente mejorable si existe verdadera voluntad política tal como se dice en la sentencia la máxima estancia jurídica europea considera contra derecho que el afectado no pueda recurrir

por la que se desestima su oposición a la ejecución hipotecaria algo que sin embargo sí está permitido a la entidad financiera cuando recurre la paralización

tal situación provoca que la protección al consumidor sea en estos casos incompleta e insuficiente por lo que el proceso según se dice y es así disminuye la efectividad de la protección al consumidor es decir que los ejecutados tienen menos

a decisiones desfavorables por ello el tribunal pide que los afectados en un desahucio puedan oponerse a una resolución judicial desfavorable en igualdad de condiciones que los bancos para lo que sería necesaria una reforma de la ley de enjuiciamiento civil han sido muchas las iniciativas que upyd ha presentado en el congreso de los diputados para luchar

proposición de ley relativa a la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes

de las hipotecas propuesta de ley de segunda oportunidad iniciativas varias para acabar con las cláusulas

enel congreso de los diputados entre otras la mayoría de las cuales han sido tumbadas por el grupo que apoya al actual gobierno de españa otros grupos también han venido presentando del mismo tipo o parecidas iniciativas

el partido popular se ha mostrado reacio a admitir esas propuestas que pretendían hacer frente

la legislación española que resulta contraria al derecho comunitario cosa que el gobierno de españa deberá en breve en este sentido es interesante en nuestra opinión que instemos mayoritariamente al gobierno de españa a atender de manera inmediata las sentencias que han venido de europa o que vengan de europa en el futuro pero también consideramos fundamental que el gobierno de españa atienda las reivindicaciones de los grupos de la oposición los cuales como decía antes

perfectamente razonables que han sido rechazadas incomprensiblemente por el partido popular además de esta adecuación legal que el gobierno de españa deberá llevar a cabo de hecho al parecer está en ello aunque la unión europea definitivo nos parece importante que los representantes políticos vascos trabajemos permanentemente en esta materia proponiendo

tiene solución si se actúa eso sí con responsabilidad

a día de hoy pensamos que es fundamental que los representantes políticos estemos atentos a los problemas concretos que pueda sufrir la ciudadanía a la que representamos

como a las asociaciones que luchan contra esta lacra de modo que podamos tomar soluciones ágil y rápidamente de ahí nuestra parte

para que se ajuste al derecho comunitario por otro lado instar al gobierno de españa a impulsar todas las reformas legales que sean necesarias para luchar esta lacra y finalmente lo que proponíamos era acordar entre todos nosotros la constitución de una comisión especial de lucha permanente

finalmente este último no va a ser posible no había acuerdo había una mayoría de grupos que no veían esta opción como factible por diferentes causas y vistas las enmiendas

era favorable a esta posibilidad a la constitución de una comisión especial de lucha contra los desahucios aquí en el parlamento vasco puesto que no había apoyo suficiente

un texto que sea lo suficientemente interesante y pueda aportar las suficientes ideas y propuestas para que

finalmente para algo pero quiero explicar qué era lo que nosotros proponíamos con esta idea que finalmente no hemos incluido en la transaccional

especial de lucha contra los desahucios en el propio parlamento nosotros queríamos

exclusivamente en la dramática cuestión de los desahucios capaz de actuar de manera diligente y rápida para escuchar y atender a ciudadanos amenazados por desahucios inminentes capaz de actuar de manera diligente y rápida para escuchar y atender a ciudadanos también ya desahuciados capaz de reunirse periódicamente para atender la reivindicaciones de determinadas asociaciones colectivos y plataformas que luchan

capaz de estudiar y proponer medidas preventivas capaz de reunirse de manera periódica para tratar monográficamente sobre posibles modificaciones legales

cada cual en el uso de sus competencias en este parlamento en los últimos años ha habido muchas ponencias distintas y muchas comisiones especiales diferentes a nosotros nos parecía esencial que un asunto tan

pues también tuviera como respuesta la constitución de una comisión que tratara específicamente este asunto

y por eso hemos preferido aparcar esa idea ya digo que vistas las enmiendas no era posible por lo tanto esa era nuestra idea

es sobre todo modificar las leyes injustas y en concreto aprobar cuanto antes y por parte del gobierno de españa algo que consideramos muy importante como es una ley de segunda oportunidad para las familias como le hemos venido reclamando permanentemente

de aquí va a salir esto que yo considero muy importante que este parlamento pida al gobierno de españa que apruebe cuanto antes una ley de segunda oportunidad

y dramático que personas que se vieron atrapadas por la burbuja inmobiliaria y por la crisis económica se vean perseguidas por esas deudas impagables toda su vida

injusto y dramático y esto se puede solucionar a través de la modificación de las distintas leyes en vigor

que se apruebe cuanto antes una ley que garantice una segunda oportunidad para los deudores hipotecarios insolventes

o por la de la ley de enjuiciamiento civil o por cualquier otra similar que incentive la renegociación de una hipoteca o la dación en pago

semejante una segunda oportunidad para el deudor de rehacer su vida económica y disfrutar de una vivienda en fin finalmente hemos

con el grupo nacionalistas vascos y con el grupo socialistas vascos ahí se recoge lo fundamental de lo que cada uno de nosotros proponíamos y ya digo que se incluye también

una ley de segunda oportunidad es posible que el gobierno no atienda esta reivindicación ya en el congreso otros grupos una mayoría de grupos lo han venido planteando pero en todo caso me parece interesante que este parlamento por primera vez solicite algo parecido y también se incluye en esta transaccional el compromiso de este parlamento de trabajar para acabar

de este parlamento para atender las reivindicaciones de las asociaciones y plataformas que trabajan contra esta lacra en la enmienda planteada por el grupo eh bildu venía a defender que los postulados

que se presentó en el congreso de los diputados yo lo único que puedo decir es que nosotros dimos a esta toma en consideración de aquella ilp y puesto que

acabó como acabó es posible que sea una buena referencia aquella ilp sin duda

elementos muy interesantes pero creo que también es muy interesante lo que planteamos en esta transaccional que una mayoría de grupos hemos firmado creo que es posible y sería deseable que todos los grupos de la cámara votaran a favor de esta transaccional he venido con la idea de

posible espero que el consenso si no unánime

unanimidad tan deseable en un asunto como este que parece que tiene menos relevancia o repercusión mediática pero que creo que es tan importante o más
que otros que habitualmente tratamos gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta egun on guztioi volvemos a debatir en esta cámara

en qué vez vamos el asunto de los desahucios y que no es tampoco baladí que se vuelva a debatir creo

que si los debates sirvieran lo que pasa es que yo creo que en muchas ocasiones no le sirven a los ciudadanos y no les sirven para afrontar y yo también lo quiero decir aquí

es evidente que la vivienda no es

de la vivienda un desahucio provoca y produce un impacto emocional considerable

y a su familia y cualquier persona

sensibilidad tenemos que empatizar y somos capaces de comprender las consecuencias

y han sido cuantiosos los desahucios porque parece que los desahucios han aparecido en el año dos mil once cuando entra el gobierno del partido popular no han sido cuantiosos los desahucios desde la llegada de la crisis

un crecimiento exponencial de los mismos y en la mayor parte de los casos

ya que la pérdida del empleo ha sido el factor desencadenante en la mayor parte

el actual gobierno de españa está siendo objeto de muchas críticas en torno a este asunto pero hay que decir que es el gobierno de españa el que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico una legislación para la protección de los deudores hipotecarios y para la protección de los usuarios

en especial vulnerabilidad la legislación aprobada

y para ello establece principalmente un sistema basado en la reestructuración de la deuda el objetivo que debemos tener todos es ofrecer un marco

y pueda evitar así ser desalojado de su vivienda lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar ahora el partido popular aboga por el cumplimiento de las obligaciones aunque haya en algunos casos que para ese cumplimiento establecer

nosotros no promoveremos ni fomentaremos esas posiciones que lo que dicen es que no se cumplan las obligaciones hay algunos que cuando gobernaban

defendían a ultranza el cumplimiento de las obligaciones

y han cogido la bandera del incumplimiento como los primeros por ello

hipotecarias hemos de expresar también que el gobierno de españa ha sido el primero en legislar en esta materia y también en una materia

el partido socialista y como seguro que algunos van a decir que no los datos están ahí cuándo se produjo el mayor número de los desahucios y el mayor aumento de las deudas hipotecarias fueron en los años en los que gobernó el partido socialista es verdad que podíamos estar hablando de la normativa de los desahucios en general porque la verdad es que es muy considerable pero aquí concretamente en principio o este grupo consideraba que se venía a hablar de un aspecto específico que era

que traía dos propuestas me voy a referir primero a la segunda es verdad que nosotros y por eso lo hemos puesto en nuestra enmienda

que se puede crear una comisión para ver qué es lo que se puede realizar lo que ocurre es que parece que algunos cuando tienen que realizar otros no tienen ninguna pega pero cuando las cosas se tienen que realizar aquí ya la cosa es diferente pero bueno se ha quitado de la enmienda de transacción que se ha hecho

puesto en la enmienda de transacción porque muchos de ellos ya se han debatido aquí lo que pasa es que hay algunos grupos

para meter cualquier iniciativa pero además para hacerlo

de cargar contra el gobierno de españa porque ese es su objetivo fundamental y sobre todo es el objetivo fundamental de algún grupo que tendría mucho por lo que callar en este asunto y me voy a referir ahora al segundo punto al primer punto perdón de la iniciativa original

de la adaptación de la legislación nacional a la sentencia del tribunal de justicia pues bien la sentencia del tribunal de justicia de diecisiete de julio del dos mil catorce declaraba

en relación con el artículo cuarenta y siete de la carta de derechos fundamentales de la unión europea debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución como el controvertido en el litigio principal que establece que el procedimiento de ejecución hipotecario no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo

juez que en su resolución final podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor en la medida en el que este

contra resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución mientras que el profesional acreedor ejecutante sí puede interponer recurso de apelación contra resolución

esto es lo que decía la sentencia y esta sentencia exigía

bien que se retire el recurso de apelación previsto en el artículo seiscientos noventa y cinco punto cuatro de la ley de enjuiciamiento civil

que se permita también al deudor hipotecario que haya invocado una cláusula abusiva recurrir el auto que no aprecie la existencia de la misma esto es lo que dice la sentencia pues bien el gobierno mediante disposición final tercera del real decreto ley once barra dos mil catorce de cinco de septiembre

uno barra dos mil de siete de enero de enjuiciamiento civil en el sentido señalado por la sentencia

pueda interponer recurso de apelación contra el auto que no aprecie la existencia de cláusula abusiva que contribuya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible así y para que quede más claro la nueva redacción de la ley de enjuiciamiento civil ha quedado de la siguiente forma

podrá interponerse recurso de apelación pues muy bien ya está visto que el gobierno de españa ha cumplido esa sentencia y ha modificado la legislación

que el tribunal hacía sobre la violación del principio de igualdad de armas íntimamente ligado al principio de tutela judicial efectiva de la que

vemos por lo tanto que a pesar de lo que aquí se dice el gobierno de españa ha adaptado la legislación al mandato de lo dictado por el tribunal europeo de justicia y por tanto las críticas que se han hecho a este respecto creemos

también con relación a la directiva porque ya la tratamos aquí a pesar de que hoy se vuelve a poner en la enmienda de transacción ya lo tratamos aquí ya les dije también en esa ocasión que muchas muchos puntos de los que se establecía en la directiva

era o muy similar o iba incluso más allá y alguna de las cosas que aquí se

habían sido denegadas cuando se defendió la directiva en europa porque en europa se dice una cosa y aquí se dice la contraria y uno no se pone ni rojo

el gobierno de españa ha demostrado seriedad y sensibilidad con este tema intentando atajar una problemática social sobrevenida cuyos responsables políticos como he dicho antes

legislativasa un problema ha querido proteger a los más vulnerables y lo ha hecho sin grandes alharacas mediáticas como corresponde a un gobierno que debe gobernar y gobierna pensando en el interés general

qué más quisiéramos pero las medidas han beneficiado a muchas personas

se han visto beneficiadas por las medidas que el gobierno puso desde la entrada en vigor de las mismas en seis mil quinientos casos se ha procedido a la reestructuración de la deuda y en otros dos mil doscientos se ha acordado la dación en pago a ello hay que sumarse

es evidente como decía que esto no es suficiente pero pone muy a las claras que el gobierno ha actuado que el gobierno ha legislado

se han beneficiado de esa acción del gobierno pero el ejecutivo no cae en la resignación y sigue trabajando y es verdad que yo no hubiera tenido ningún problema en esa ley de segunda oportunidad instar aquí al gobierno para que la tuviera en cuenta porque cuando eso se planteó no se dio un portazo lo que se dijo

oportunidad y lo expresaba al comienzo de mi intervención

relacionados con el desempleo el gobierno de españa trabaja diariamente precisamente para intentar solucionar esto ofrecer un puesto de trabajo

situación de desempleo porque el empleo es el mejor antídoto contra la exclusión y contra los desahucios y las políticas activas que se vienen desarrollando comienzan a dar sus frutos

no nos resignamos y el gobierno de españa no se resigna va a seguir trabajando y lo que solicitamos al resto de las formaciones políticas es voluntad constructiva y no
instrumentalización de un drama como este nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

gracias presidenta me ha parecido muy interesante su intervención señora llanos porque yo creo que revela como poco

a su grupo al gobierno español y todo lo demás ustedes tienen una gran sensibilidad eso acaba de decir y yo en principio me lo creía

del desempleo y luego han añadido que ustedes son partidarios pese a todo de que se cumplan las obligaciones pese a las circunstancias sobrevenidas e incluso

de cláusulas abusivas me ha quedado claro cuál es el espíritu que anima al partido popular en la sesión de veintiuno de noviembre de dos mil trece

nuestro grupo en el que se valoraba positivamente el proyecto entonces de primera directiva europea destinado a regular los prestamos hipotecarios y que en aquel momento se hallaba en fase de propuesta entonces el acuerdo que se adoptó era instar al gobierno que tan pronto se aprobara dicha propuesta de directiva el gobierno la traspusiera

aquella proposición no de ley en el acuerdo adoptado que el parlamento instaba a la concreta modificación de la ley hipotecaria ley de enjuiciamiento civil ley de regulación del mercado hipotecario ley de disciplina de intervención es decir

adaptación de la legislación española a las fuentes europeas a las fuentes de derecho europeas

uno tiene o que su grupo tiene cuando saca adelante un acuerdo que insta al gobierno español es una satisfacción muy limitada ciertamente porque ya hemos podido ver que el gobierno español por lo menos en lo que llevamos de conocimiento de su trayectoria

a ensanchar los derechos a proteger a los consumidores porque además es que esto

más allá de que lo vea bien o mal viene dado

luego la diligencia con lo que hace pues ya vamos viendo cuál es ahora por iniciativa de upyd se vuelve a traer

y aunque vamos a volver a alcanzar acuerdos le van a instar a un gobierno que es refractario

la sociedad de nuestros días y que ni siquiera la evolución del derecho europeo constituye un estímulo para modificar

si se trata de políticas de austeridad de recortes en eso sí que el gobierno es un alumno aventajado el tribunal de justicia europeo dictaminó el catorce de marzo que las leyes españolas sobre desahucios vulneraban la normativa comunitaria esto ya se ha dicho aquí en concreto la directiva noventa y tres barra trece

que sigue insistiendo el tribunal europeo que son insuficientes lo cual quiere decir que

esas adaptaciones son muy cicateras no quieren encontrar el espíritu amplio que esas directivas plantea en este caso la del noventa y tres sobre cláusulas abusivas y no será por falta de iniciativas que las ha habido

de los diferentes grupos en concreto el partido socialista el grupo socialista el cinco de diciembre del dos mil trece propuso una proposición de ley sobre medidas ante la insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento

una ley concursal personal una ley de segunda oportunidad homologable a la que tienen otros países porque verá

procede precisamente de que las garantías hipotecarias no contemplan la propiedad

actuales y futuros del deudor lo cual condena a mucha gente a vivir en una situación de furtivismo de semiclandestinidad y de perpetua

por siempre entonces una ley de segunda oportunidad homologable digamos con el acerbo comparado sería deseable no se sí la que presentó el grupo socialista

era la mejor pero solo fue apoyada por los grupos de oposición y no por el grupo de gobierno que por supuesto estas cosas les suenan a música celestial

hasta hace poco las ejecuciones hipotecarias derivadas de contratos

en esa modificación que ha comentado la señora llanos es verdad el recurso de apelación treinta días pero a nosotros nos parece claramente insuficiente entendemos que ese plazo tendría que ser mayor eso por ceñirnos al objeto del debate lo que pasa es que realmente este es un asunto que daría pie a como se ha hecho en el punto anterior a hablar de muchas cosas más

al objeto del debate hemos suscrito una transacción que seguramente no acertará en todos sus términos pero que es posibilista que plantea el objeto principal de esta iniciativa gobierno español si usted es tan sensible si usted es tan protector de los derechos de los consumidores

adapte el ordenamiento a esas directivas cumpla con esas resoluciones de los tribunales y hágalo con generosidad hágalo

le recuerdo señora llanos que estos son tiempos muy malos para no dar un ejemplo de esa naturaleza eskerrik asko itsaso jauna

sí gracias presidenta más allá de que finalmente es cierto que esta transaccional

distinta de lo que se proponía inicialmente creo que en este caso concreto ha sido para mejor y finalmente esta transaccional

un avance en relación a determinados posicionamientos de determinados partidos políticos en debates anteriores que

surja una mayoría de esta cámara que pida al gobierno de españa que apruebe una ley de segunda oportunidad creo que ya es motivo suficiente para que al menos upyd se sienta plenamente no sé si plenamente pero al menos muy satisfecho

de este debate por lo tanto lo que se propone en esta transaccional es por un lado instar al gobierno de españa a cumplir los requerimientos de la unión la señora llanos nos decía que como consecuencia del último decreto aprobado ciertamente el día cinco de septiembre de este mismo año ya se cumplen los requerimientos planteados por el tribunal europeo esto no está claro que sea así porque lo que sabemos a día de hoy es que la comisión europea

con la modificación de este decreto la normativa española cumple los requerimientos establecidos en esa sentencia

yo creo que en el fondo lo triste es que sentencias europeas tengan que decir al gobierno de españa qué es lo que tiene que hacer yo creo que

es esta porque aquí ya se ha dicho han sido cantidad de iniciativas planteadas por distintos grupos las que han sido rechazadas de manera absolutamente incomprensible

en el congreso de los diputados ha habido grupos de todo tipo que han planteado iniciativas ciertamente interesantes e incomprensiblemente el partido popular ha venido reiteradamente votando en contra y ya digo eran iniciativas perfectamente nosotros no solamente nosotros hemos presentado alguna iniciativa relacionada con la aprobación de una ley de segunda oportunidad que creo que es el instrumento

esencial para solucionar muchos de los dramas existentes esa ley de segunda oportunidad

en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno y que sin embargo aquí no se termina de aprobar y ya digo a pesar de que los grupos de la oposición

exigiendo por lo tanto nos sentimos satisfechos en relación a la iniciativa legislativa popular que se presentó en el congreso de los diputados yo tengo que decirle a la portavoz del grupo eh bildu que nosotros votamos a favor de la toma en consideración de esa ilp y que muchos de los planteamientos planteados en esa ilp nos parecía perfectamente razonables

no todos pero una gran mayoría de ellos sí por eso fue que presentamos las correspondientes enmiendas para tratar de mejorar esa ilp pero nuestra posición fue favorable a la toma en consideración de esa ilp decía la señora llanos que los desahucios no han empezado con el gobierno del pp y es absolutamente cierto pero lo importante es que a día de hoy los desahucios continúan

es instar a ese gobierno a que no diga que se muestra sensible ante los dramas existentes sino que actúe no basta con

en vigor para hacer frente a este drama independientemente de lo que hizo en el pasado

no hizo prácticamente nada o directamente nada esto es cierto pero nosotros no queremos tampoco entrar en estas luchas partidarias los miembros del partido socialista conocen

efectivamente durante largos años dieron la espalda a este problema

nuestra obligación es atender o pensar quién es el partido político que gobierna ahora y el que gobierna ahora es el partido popular y por lo tanto a este nos dirigimos por otro lado la señora llanos nos remite

y lo cierto es que su respuesta digamos que ha sido muy parecida a la que nos dio ayer la ministra la interpelamos en relación a la puesta en marcha de un plan por parte del gobierno de españa para luchar contra la pobreza infantil y se nos dijo esto se solucionará cuando salgamos de la crisis y cuando se cree empleo pero la pregunta es y mientras tanto qué esta es la cuestión porque la salida de la crisis puede durar unos cuantos años más y la creación de empleo puede costar

y por lo tanto no hay que esperar a esa salida de la crisis hay que actuar ya y una cosa tan razonable y lógica como la aprobación de una ley de segunda oportunidad depende de la voluntad política del gobierno de españa hasta ahora no la ha tenido más allá de que la señora llanos diga que son sensibles

hay que actuar y esto es lo que nosotros proponemos en definitiva más que palabras hechos la transaccional creo que es positiva seguro que
no es suficiente pero creo que es un paso importante agradezco a los grupos que lo han firmado y a todos los grupos que vayan a apoyarla gracias eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta bien se ha hecho alusión a que yo haya hecho

al tema de la sensibilidad y por supuesto que la tenemos pero la sensibilidad que ha tenido el gobierno de españa no ha ido no se ha quedado en la sensibilidad

según entró el gobierno del partido popular empezó a tomar medidas según entró y es verdad

que quedan cosas por hacer es verdad y es verdad que hay un gran número de desahucios es verdad

que el ochenta por ciento de los desahucios se produjeron en la época socialista en la época socialista y que el crédito pasó de setenta y ocho mil millónes

dónde estaban es que no es cuestión de hacer partidismo con este tema señor itxaso pero es que lo que

lo que es lamentable es que pasen del gobierno a la pancarta en cero coma dos que durante

no había cláusulas abusivas no había desprotección de los deudores hipotecarios y dónde estaban dónde estaban ustedes

qué hicieron y usted nos dice que nosotros miramos para otro lado y ustedes para dónde estaban mirando para atrás

y usted viene hoy aquí enarbolando una bandera como que vamos hay que hacer y por qué no hicieron ustedes algo porque el gobierno del partido probablemente quedan muchas cosas por hacer y hay que hacer cosas seguro y yo soy la primera que se lo demanda a mi gobierno y hay que hacer cosas

pero y ustedes qué hicieron cuando estaban

tiene unos cuantos años existía desde hace mucho tiempo ni en la primera época ni en la segunda en ninguna de las dos

aquí usted viene a decir que nosotros hacemos política refractaria pues no sé si será refractaria pero por lo menos hacemos política ustedes ni eso

nada eso sí yo lo de la directiva

yo lo dije la otra vez y se lo voy a leer aquí que la directiva europea tenía muchas similitudes con la normativa española

un manuscrito donde el comprador reconoce haber sido perfectamente advertido de los riesgos que conlleva y que incluso el notario puede cesar la firma o interrumpir la firma si se ve que hay cláusulas abusivas

hay una limitación de la concesión del crédito hipotecario en un ochenta por ciento

el gran problema que ha habido y en cuanto a la dación en pago

la nueva directiva expresa que la legislación no se podrá poner a la dación en pago

en nuestra normativa luego es que es más nuestra normativa iba en algunos aspectos la normativa que introdujo el partido popular iba

mucho más allá de la propia directiva pero es que y se lo digo la dación en pago que ustedes han estado a favor

y aquí en europa el ponente de esta directiva del partido socialista el señor antolín dijo que la dación en pago forzosa agravaría los problemas y ya le he dicho alguna vez a usted

política de fiestas y ustedes aquí ahora verdad los primeros me parece muy bien que lo hagan cada uno puede hacer lo que estime conveniente pero eso es instrumentalizar simplemente para desgastar al gobierno

anteriormente y desde luego nosotros usted rechaza la política refractaria nosotros rechazamos esa forma de hacer política y con relación al cumplimiento de las obligaciones claro que estamos eso no quiere decir que no haya que ayudar y se lo he dicho

se puede solicitar una quita de un veinticinco por ciento que eso ya reduce la obligación pero lo que no es responsable es que un gobierno

a nosotros no nos parece responsable en absoluto y con relación al empleo es verdad que el empleo no es la única solución es verdad que hay desahucios que se producen por causas que son ajenas al desempleo pero también estarán conmigo en que la mayor parte de los desahucios ha habidos en estos años han venido vinculados indefectiblemente con la falta de empleo y que si se soluciona

el problema aminorará muchísimo al margen de otras consideraciones que el empleo

que hay que seguir protegiendo a los deudores hipotecarios desde luego y nosotros mire nos vamos a abstener en esta normativa yo le digo señor maneiro que yo la suya

consideraba que usted establecía como que no hacía el gobierno de españa nada y yo lo que le venía a decir es que siguiera haciendo

no me la hubiera admitido hubiera votado a favor de su iniciativa lo que ocurre es que usted prefería

mezclar determinadas cuestiones cuestiones que ya se han debatido antes y cuestiones que se han incluido aquí

un único objetivo que es hacer oposición al gobierno de españa nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

al gobierno del partido popular no hace falta que le desgaste nadie yo creo que él mismo se desgasta solo se desgasta y gasta sobre su sensibilidad mire

entre las muchas iniciativas que ha habido hubo una iniciativa legislativa popular modalidad a la que ustedes ahora se adhieren con gran entusiasmo bueno esa iniciativa legislativa popular registró

pretenden recabar es muy superior bueno pues sabe qué hicieron con esa iniciativa legislativa popular un cucurucho entonces

la sensibilidad de ustedes queda puesta absolutamente de manifiesto

es su capacidad para despejar incógnitas que nadie más hasta ahora había despejado porque usted habla del reparto de los desahucios por etapas de gobierno para mire yo no tengo ninguna nostalgia de la percepción

claro que sí no vamos a repetir el latinajo errar es humano claro que sí pero usted está atribuyendo no sé exactamente desde qué fuentes datos que yo a contrastar le diré ninguna fuente puede establecer con meridiana aproximación en número exacto pero a una pregunta del diputado señor lara cayo lara el gobierno de españa

manifestó que con los datos del consejo general del poder judicial el resultado desde el dos mil seis claro también podríamos ir hasta biriato pero en principio cogemos este

en el año dos mil siete diecisiete mil cuatrocientos doce en el dos mil ocho hogei mila bostehun eta berrogeita bederatzi en el dos mil nueve treinta y siete mil seiscientos setenta y siete

en el dos mil diez cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta

entonces señora llanos no sé de donde saca usted esos datos sí

comprendo su nerviosismo y su malestar lo comprendo

y en el asunto que hoy nos ha traído no era tan difícil no era tan difícil despachar el asunto diciendo gobierno de españa

de otras instrucciones de política fiscal

tan cumplidor en esos menesteres por qué no aplica también las directivas y las resoluciones de los tribunales que hacen referencia a otras cosas

y eso es algo de lo que ustedes son conscientes y precisamente por eso ese estado de alteración que me ha parecido advertir en usted señora llanos creo que solo denota realmente la inconsistencia que hay

con sensibilidad social que yo francamente no la veo por ningún lado y los hechos la acción de gobierno que en este caso es por omisión por omisión además sí por omisión de no ir señora llanos señora llanos que el año pasado

que aquella directiva que regula precisamente los contratos hipotecarios la primera vez que se regula en europa eso que entonces era propuesta que por favor que la traspusiera a la mayor brevedad que todas esas cosas van a venir en favor y auxilio de los deudores hipotecarios bueno en fin eso llevará su tiempo claro que sí

pero cuando estamos ante una situación de urgencia cuando vemos los casos que vemos cuando nos retransmiten a diario las situaciones ahora mediáticamente ese asunto parece que ha cedido su puesto a otras cosas

y que hay que legislar en diferentes frentes y nosotros los socialistas con tantos errores tratamos efectivamente de purgarlos subsanándolos mejorando las posiciones

propuestas que de alguna manera respondan a las demandas de los ciudadanos y sobre todo de aquellos que se encuentran más desfavorecidos y perjudicados

le diré que otras instituciones como jueces por la democracia y el banco de españa

que la cláusula suelo por ejemplo que se retire se sigue practicando y eso supone también un menoscabo importante en la economía de las familias
el gobierno otro cucurucho eskerrik asko

para visibilizar la miseria humana de las miles y miles de personas que no piden marcharse de sus países de origen que son expulsadas por nosotras

incluyendo sus derechos más elementales pocas veces una imagen ejemplificar tan bien la desigualdad norte sur

quienes nada tienen y solo pueden perder la vida y quienes miran para otro lado porque es una realidad que les interpela directamente

personas fallecidas que dejaron sus sueños en una patera en los últimos diez años en octubre del pasado año trescientos personas perdían la vida en lampedusa y el seis de febrero de este año

ousman larios daouda nana y otras tres personas más

perdían la vida de la manera más cruel que hayan podido imaginar siendo el estado español el responsable directo de estas muertes a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad por acción a través de ciento cuarenta y cinco pelotas de goma y cinco botes

y por omisión de socorro dejando morir a estas quince personas

en las fronteras y por supuesto en su defecto depurar responsabilidades aportaron para ello numerosos testimonios de los que sobrevivieron a esta tragedia uno de ellos explica cómo él mismo fue golpeado por una bala en la espalda y por otra en la cabeza

golpeándole con las defensas de goma estos golpes le causaron lesiones en diversas partes de su cuerpo

que mientras estaba siendo detenido en la playa vio las bolas de goma impactar contra las cabezas y flotadores de tres de sus compañeros y cómo con posterioridad

este chico explicaba la gravedad de esta situación pues detalla el gas

sus compañeros bebían agua es decir al perder el conocimiento se ahogaban en el mar las declaraciones recogidas por los colectivos denunciantes hablan de la presencia de un barco de la guardia civil en el agua a bordo de este barco una persona con un palo largo

para evitar que alcanzaran la costa española además uno de los testigos añade

en dirigirse a la costa española los golpeaban en la cabeza otro testigo menciona que algunos de sus compañeros

y cuando volvió comenzaron a dispararles desde la organización caminando fronteras elaboraron un informe basado en las entrevistas realizadas a los supervivientes de la tragedia

coinciden en un testimonio en una relación causa efecto entre las personas fallecidas y heridas y el uso de material antidisturbios una de las conclusiones que más impacto me generó es la existencia de serias dificultades para la identificación de estas personas fallecidas en los estados español y marroquí donde encontraron los cuerpos ante la imposibilidad de tomar fotos y enviarlas a los posibles familiares para su identificación

de los cuerpos en el estado español sin dar tiempo a las familias de las personas desaparecidas para poder reclamar los cadáveres y enterrar sus cuerpos conforme a sus costumbres el ministerio del interior del estado español

habla de no haber existencia de material antidisturbios de imágenes de lo ocurrido que los que murieron no sabían nadar que después

posteriormente a las muertes de estas personas algo que después tuvieron que desmentir por la evidencia de los hechos

con montajes burdos de videos que sitúan a personas subsaharianas agrediendo guardias civiles en franjas horarias distintas afortunadamente tenemos videos que corroboran que el gobierno del estado español miente y que sus políticas migratorias son asesinas es tan invisible lo que sucede en las fronteras de ceuta y melilla que salvo por organizaciones que realizan una

viajar a cualquiera de estas ciudades autónomas para darte cuenta que lo allí sucede tiene nombres y apellidos trata de personas

supera la ficción esto es lo que pudimos comprobar en el viaje que el pasado mes de julio realizamos a melilla como parte de la delegación de derechos humanos invitadas por una ong por cear euskadi en una investigación específica en lo que han denominado ellas

en este viaje pudimos conocer de cerca el accionar de los reinos torturadores del estado español y marruecos y esas vulneraciones sistemáticas de derechos humanos

cuando hablamos de melilla automáticamente se nos vienen a la cabeza las intencionadas imágenes de avalanchas de africanos que intentan cruzar la vallas

con la nueva valla que está construyendo marruecos con unos costes económicos de setenta y dos millónes de euros en los últimos ocho años y digo africanos porque en su mayoría

siendo por supuesto esto invisible ante los medios de comunicación o bien llegan en pateras

el primer factor a destacar es el género una vez más las mujeres migrantes y refugiadas se llevan la peor parte todas ellas víctimas de reiterados abusos sexuales de origen a destino la mayoría víctimas de trata con fines de explotación sexual en redes que controlan su trayecto migratorio además de la violencia machista intrafamiliar que parecen

etcétera todo ello con amenazas de muerte y algo que es mucho peor para ellas la amenaza del vudú esto

sin obviar que además proceden de países en situación de conflicto de guerras de graves crisis humanitarias lo cual se supone que ya está sujeto a la protección internacional

como causa de asilo así que directamente pasan a regirse por la ley de extranjería donde necesariamente hace falta una denuncia

por tanto estas mujeres se encuentran desprotegidas y corren el riesgo de ser devueltas a sus países de origen quienes llegan a melilla

y no pueden circular por tanto libremente por la península y prefieren esperar y salir para poder desplazarse hacia la península por cualquier

el problema es que llevan consigo además una orden de expulsión convirtiéndose inmediatamente migratizando a estas personas a estas personas refugiadas convirtiéndolas en una persona inmigrante en situación administrativa irregular sometida por supuesto a la mayor precariedad social económica y vital y por tanto con mayores dificultades para retomar el derecho al asilo otro factor relevante

hemos tenido acceso hemos podido visitar el centro de estancia temporal de melilla y hemos podido constatar como viven

en un centro que tiene capacidad para cuatrocientos ochenta personas cuatrocientos de ellas menores y con una estancia mínima de doscientos ochenta días y este centro cuenta con solo quince personas funcionarias para mantenerlo

responsabilidad directa del ministerio del interior del estado español

alguien de verdad puede creer que los saltos de la valla son incontrolables cuando nos encontramos con detectores de movimiento de calor

fuerzas de seguridad marroquíes bases aéreas estadunidenses bases aéreas españolas es sencillamente si quisieran nadie saltaría la valla pero claro cuando se firman determinados acuerdos económicos

estos saltos masivos para distraer la atención y desviarla con la miseria humana con la trata de personas

cómo conviven las fuerzas militares marroquíes estadounidenses con las personas refugiadas

afortunadamente existen medios alternativos que nos permiten conocer la realidad de la crueldad de las fuerzas marroquíes

quienes niegan la soberanía a los diferentes pueblos de la península se la ceden a marruecos para que campe a sus anchas y vulnere los derechos humanos a su antojo

y vídeos como el que hemos visto recientemente donde una persona prácticamente fallece por las palizas que le da la guardia civil y no solo eso sino que lo deja en territorio marroquí para que fallezca también debemos hablar de la esclavitud más visible de melilla las denominadas mujeres porteadoras mujeres marroquíes utilizadas para llevar

de entre treinta a cien kilos de peso por dos euros al día sin ningún tipo de control aduanero basta con darse un paseo por el barrio chino para comprobar el horror que padecen

el gobierno del estado español pretende ahora aprovechar la ley mordaza para introducir una reforma a otra ley a la ley de extranjería para que sea un procedimiento que pase desapercibido para que no se genere ningún tipo de debate ni siquiera se permita estudios enviar estudios al respecto se trata de las famosas devoluciones en caliente que el estado español está aplicando de manera ilegal y que contravienen cómo no múltiples legislaciones internacionales que vulneran los principios de no devolución y derecho al asilo

ayer mismo por los argumentos expresados anteriormente por violar el derecho

amnistía internacional recuerda que estas prácticas están prohibidas por el convenio europeo de derechos humanos y son contrarias a la convención de ginebra del estatuto de las personas refugiadas

admitiendo que el gobierno español practica devoluciones en caliente y que por tanto contraviene la normativa de la unión europea como señala amnistía internacional no se puede legalizar ilegal en el derecho internacional con estas devoluciones el gobierno español pretende o está empujando mejor dicho a estas personas a ser perseguidas torturadas desaparecidas e incluso fallecer en los países de tránsito como marruecos pero bueno esto ya está sucediendo porque ya lo están haciendo

internacional legal eliminará la responsabilidad que tiene el estado español ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas

del incumplimiento de la legislación internacional y comunitaria mugarik gabeko mundu baten alde non herrien arteko elkartasuna eta

upyd quiere destacar y defender públicamente la labor humanitaria que han desempeñado

a la hora de salvar la vida a inmigrantes en ocasiones han llegado incluso a perder su propia vida en el desempeño de esta labor esta labor humanitaria

institución que suele ser la primera en lamentar no salvar vidas o en que se produzcan fallecimientos obviamente en casos como el que nos ocupa pueden existir

si fuese necesario respondiesen por las actuaciones

por otro lado no podemos olvidar que el gobierno tiene la responsabilidad de vigilar las fronteras pero también la obligación de proteger las vidas de las personas que llegan a nuestras fronteras

del modo en el que lleguen además como país democrático tenemos el deber de defender los derechos humanos en todo el territorio y promoverlos en donde

además se muestra favorable a las declaraciones de la comisión europea sobre su rechazo al uso de métodos como los disparos con pelotas de goma contra los inmigrantes

ilegalmente se produjo una irresponsabilidad política es evidente no solo por el resultado de los hechos sino también por la mala actuación a la hora de gestionar la información ya que existieron más de siete versiones oficiales distintas que se contradecían entre sí

llevada a cabo por la guardia civil dejando de lado las responsabilidades de tipo político y desinformando y confundiendo de ese modo al conjunto de la ciudadanía

ha solicitado la elaboración de un protocolo de actuación ante la llegada de inmigrantes irregulares a las fronteras de ceuta y melilla nos parece muy apropiada

nuestra portavoz en el congreso preguntó al ministerio del interior con qué informes cuenta que avalen la efectividad de la llamada malla antitrepa que se está instalando en las vallas de

así como sobre las medidas concretas que piensa llevar a cabo el ejecutivo para garantizar el correcto desempeño

para cumplir estrictamente la ley porque pese a que los hechos tuvieron lugar hace más de ocho meses el tema sigue siendo aún de actualidad y sigue siendo necesario debatir sobre el mismo

recientemente hemos podido conocer la intención del gobierno de rajoy de modificar la ley de extranjería para dotar de valor jurídico a los denominados rechazos en frontera

para referirse a las devoluciones en caliente a marruecos de los inmigrantes que son interceptados entre las vallas existentes recientemente una ong difundió un video en el que se puede ver como un inmigrante que participó en el salto a la valla fronteriza de melilla

no habiendo recibido ningún tipo de auxilio ni de atención sanitaria a pesar de que existía asistencia médica el inmigrante fue arrastrado entre cinco agentes de la guardia civil y el cuerpo nacional de policía para ser devuelto

hechos como este a nosotros nos parecen absolutamente inaceptables se ha utilizado un lenguaje demasiado tecnocrático e inhumano para referirse a los hechos deshumanizando el drama que supone la muerte de seres humanos

en los que el número de inmigrantes allí afinados casi cuadruplica el número para el que fueron diseñados y donde cada funcionario atiende a más de cien personas estamos a favor y aún más hacemos nuestras las peticiones que desde alguna organización que

y de la unión europea en esta materia han sido lo suficientemente claras y que abogan por la defensa de los derechos humanos y el respeto de las normas internacionales y de la unión europea

democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

seguridad y justicia fundándose sobre los valores universales de la dignidad humana

la igualdad y la solidaridad mientras que el artículo tres punto cinco del tratado de maastricht afirma que contribuirá a la protección

todos estos principios y todos estos derechos son los que nosotros tenemos que defender desde dos mil ocho marruecos ostenta la condición de socio privilegiado de la unión europea

pero a cambio debe colaborar en el control de sus fronteras

a europa del mismo modo españa mantiene acuerdos bilaterales con marruecos como el acuerdo de readmisión hispano marroquí suscrito en mil novecientos noventa y dos y que entró en vigor el veintiuno de octubre de dos mil doce con estos acuerdos se puede no solo llegar a vulnerar el principio consuetudinario de no devolución sino también los valores y derechos que se han construido como pilares europea es por tanto más que nunca necesario el respeto a los derechos humanos y la correcta aplicación de la normativa internacional de la unión

reivindicamos respeto a los derechos humanos respeto a la legalidad vigente

más y mejor en aquellos países del mundo donde existe pobreza desigualdad y miles de personas se sienten desamparadas en aquellos lugares también deberíamos actuar pero en lo que al asunto se refiere

es respetar los derechos humanos de todos los individuos cosa que en ocasiones no se ha hecho eskerrik asko maneiro jauna

eguerdi on guztioi la iniciativa que debatimos hoy tiene su origen en un hecho dramático como fue la muerte el seis de febrero pasado

lo cual se inscribe en un problema mucho más amplio como es la gestión de los flujos migratorios que se está desarrollando por parte de los países de la unión europea

los socialistas somos conscientes de las dificultades que supone esa gestión máxime cuando los estados que son los primeros receptores como los mediterráneos

del resto de la unión europea pero ninguna dificultad

los derechos de las personas que pretenden cruzar las fronteras asegurar el derecho a la vida a la integridad física y moral a la dignidad y a las normas de derecho internacional y humanitario es una responsabilidad de los poderes públicos y el seis de febrero el gobierno español

acosó y atacó con métodos violentos a las personas que se encontraban en la playa de tarajal ocultó pruebas y mintió cuando dijo que no se habían empleado pelotas de goma en el agua no atendió como corresponde al derecho humanitario a quienes estaban siendo víctimas

las migraciones de personas por los más diversos motivos son una constante desde que existe la humanidad

a la intensificación de las desigualdades entre ricos y pobres y a la utilización de todo tipo de violencia las personas que emigran buscan refugio contra la violencia que sufren en sus países de origen o unas condiciones de vida que les permitan subsistir europa está mirando para otro lado en la gestión de este problema una primera acción debería darse

intensificando la cooperación al desarrollo de los mismos no como está haciendo el actual gobierno español que ha recortado el setenta y cinco por ciento de la ayuda a la cooperación en un año lo pasó de destinar ochocientos setenta y dos millónes que era lo que había en el anterior gobierno de

situándonos a la cola en el ranking de países cooperantes

decenas de miles de personas deambulan por distintos países a merced de las redes de tráfico de personas

llegan a la frontera que se supone debería constituir una liberación

de las leyes internacionales y europeas de inmigración y refugio como ocurrió el seis de febrero en ceuta como está ocurriendo constantemente en la frontera mediterránea la tercera fase del drama de la migración ocurre una vez que se ha logrado los que pueden

en españa el gobierno del partido popular ha restringido por decreto el acceso de inmigrantes a la sanidad abordar en bloque el problema implicar a la unión europea

es indispensable para paliar la tragedia que viven quienes buscan un futuro para sus vidas o simplemente huyen de la violencia de sus países de origen la solución al problema no vendrá con la utilización de la violencia las migraciones no se paran con pelotas de goma

será la aplicación de la legislación vigente tanto a nivel internacional como estatal que ya son de por sí bastante restrictivas pero que por lo menos han de ser cumplidas la solución de verdad

del derecho del otro a buscar una vida digna vallas concertinas endosadas en ellas represión cambiar la legislación para permitir las devoluciones en caliente protocolos de actuación que no tienen en cuenta las personas no van a impedir que el número de inmigrantes

este año son más de mil novecientos los que lo han hecho intervención en origen mediante la cooperación lucha contra las mafias que trafican con personas en el tránsito

implicación de la unión europea exigir a la unión europea una política común sobre inmigración son actuaciones que pueden ayudar a no convertir en tragedia la aspiración humana a buscar una vida digna en cualquier del planeta hemos firmado una enmienda transaccional con el grupo nacionalistas vascos y eh bildu en el que se reflejan todas estas consideraciones en las que después de demostrar la solidaridad con las quince personas muertas

en aquellos sucesos aquel día seis de febrero denunciamos que en aquel momento

no actuó garantizando el derecho a la vida y la atención humanitaria

también instamos al gobierno de españa a que retire la anunciada modificación de la ley de extranjería que la quiere hacer vía ley de seguridad ciudadana porque consideramos que

a solucionar el problema lo que hace es legalizar una absoluta injusticia y también queremos que el gobierno de españa respete su legalidad que si la ley de extranjería dice que se debe garantizar el derecho a la asistencia jurídica el servicio de traducción y el recurso administrativo que debe tener cada inmigrante o cada refugiado se respete porque

y por último queremos que toda la unión europea se implique sabemos que no es un problema exclusivamente del estado español

pero tenemos que comenzar todos los europeos y por supuesto el gobierno español por respetar la legalidad vigente nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

el mes de febrero como ya se ha comentado ahí en la tribuna morían quince subsaharianos cuando intentaban

hoy casi diez meses después la situación ha empeorado con la aplicación de unas políticas migratorias que contravienen la normativa internacional y de la unión europea

antes ya del mes de noviembre pues me entró un poco complejo de lentitud yo decía esto pasó en febrero

nos lo ha puesto muy fácil porque evidentemente no ha habido ningún cambio desde el mes de febrero y la política

se mantiene desde aquel fatídico día de febrero con los quince muertos la historia nos

social migratorio ninguna revolución importante se pueden detener en el tiempo con las armas y con la violencia se pueden detener temporalmente eso le puede servir

y para que pase ese tiempo cortito pero nunca va a lograr detener la emigración de este tipo siempre se habla a la hora de de que son forzosas o voluntarias

que todos los africanos que esperan detrás de las vallas de ceuta y melilla tienen motivos para que sea una emigración completamente forzosa hablamos de gentes que vienen

por raza por religión por política por motivos de nacionalidad por motivos tribales incluso por motivos también de género

no se puede detener en absoluto utilizando tan solo las armas y la violencia la policía y los militares

dos cosas fundamentales la primera que aplique la ley que aplique

y que aplique también todos los dictámenes del tribunal de derechos humanos de estrasburgo también la normativa internacional y de la unión europea y cómo no también pues que se acuerde del defensor del pueblo de madrid

hablaba que decía que eliminar las cuchillas de las vallas de melilla y todavía siguen estando puestas

las políticas de seguridad y de la lucha contra la inmigración irregular han llevado a la unión europea a externalizar sus fronteras

que dificulta la llegada de las personas necesitadas de protección internacional y que ha convertido la huída en una nueva forma de violencia el estado español como frontera del sur de europa ha desarrollado su sistema de control de flujos migratorios llevando su jurisdicción más allá

y estableciendo acuerdos con los países de origen para que controlen la salida de personas con sus propias costas la agencia europea para la gestión de la cooperación operativa de la frontera las patrulleras en aguas internacionales los centros de detención en terceros países como libia o mauritania las vallas y las cuchillas de ceuta y melilla los acuerdos de readmisión los centros de internamiento para extranjeros y los vuelos de deportación

este continuo y creciente endurecimiento de las políticas migratorias ha supuesto por un lado la disminución de la llegada de embarcaciones a las costas españolas y en consecuencia y entre comillas

también ha significado un notable aumento de las muertes y desapariciones durante los intentos de alcanzar territorio europeo al obligar a las personas refugiadas

han muerto diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro personas en su intento por alcanzar la frontera europea y de ellas más de ocho mil han desaparecido en la mar a pesar del incremento de las entradas irregulares en ceuta y melilla en el año dos mil trece el volumen migratorio en la frontera sur

respecto al conjunto del movimiento migratorio hacia el estado español supone únicamente el cuatro por ciento de las entradas irregulares en la unión europea pero sin embargo

son de enorme contundencia rádares sensores cámaras térmicas

aviones helicópteros barcos y patrullas nosotros con esta enmienda pactada con los socialistas y con bildu repito lo que decía antes sintetizar en dos aspectos la petición al gobierno de españa el primero que la historia indica que con violencia y con represión no se arregla absolutamente nada y la segunda que tienen tribunales internacionales y una ley propia de extranjería que deben aplicar porque llevan bastantes meses

que la frontera de un país europeo del siglo veintiuno besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramírez escudero jauna

que quiero hacer y el previo porque parece que aquí solo algunos son los

es que evidentemente este grupo político y el gobierno de españa

el que traía motivo de la proposición que es la situación de ceuta y melilla y dada la situación geográfica de españa y especialmente como digo la de ceuta y melilla llevan años sometidos a una presión migratoria y así

pasar a estas dos ciudades este año y dos mil lo han conseguido

en el que cientos de inmigrantes intentaron cruzar la frontera que separa marruecos y españa a través de los dos fronterizos se produjo una avalancha y finalmente es verdad se produjeron unas muertes que también desde aquí queremos

y desde luego nuestro absoluto pesar por la pérdida de esas vidas humanas se abrieron diligencias es cierto en un juzgado de instrucción

concluyeron con el archivo de las mismas esta proposición no de ley es presentada en esta cámara el doce de febrero un día antes de la comparecencia

del interior en el congreso de los diputados para explicar los hechos pero es normal que se presentase antes porque daban igual las explicaciones daban igual las explicaciones o la clarificación de los hechos la petición el contenido de esta proposición es bien distinto

es atacar al gobierno utilizando cualquier tipo de argumentos aunque suponga instrumentalizar el sufrimiento

actuaciones por una forma de proceder que no es propia y exclusiva de este gobierno

y darle continuidad tal y como se puso de manifiesto en la comparecencia en el congreso de los diputados es necesario hacer compatible la seguridad de las fronteras exteriores de españa y por extensión de la unión europea con una política migratoria ordenada humanitaria y adecuada a las exigencias del derecho internacional de la normativa europea y de nuestro ordenamiento y eso

es lo que defiende el gobierno de españa las fronteras de ceuta y melilla deben estar eficazmente protegidas deben cumplir el mandato que pone europa aquí hemos estado hablando en otros puntos de la normativa europea y de importancia de europa y de cumplir esa normativa que viene de europa pues bien el código de fronteras de schengen de dos mil seis establece

y las establece además porque cualquier vulnerabilidad de las mismas sería aprovechado inmediatamente por las mafias cuyo negocio es el tráfico de seres humanos

violentas los hechos fueron explicados pormenorizadamente en el congreso y aquí no se ha

las explicaciones o las versiones de otros grupos y por lo visto la versión del gobierno sin embargo no es digna

que sobre las cinco cuarenta y cinco se detectó un grupo de doscientos inmigrantes que se acercaban al vallado y que a las siete treinta de no ser interceptados se dirigirían

este grupo daba muestras de una actitud violenta agrediendo con palos y lanzamientos de piedras al ejército marroquí

sí se reconoció la utilización de material antidisturbios siempre desde tierra a una distancia de más de veinticinco metros porque cuando

se dio la orden tajante de cesarlo la actuación de la guardia civil fue profesional y sin improvisación dirigida por

especializados en este tipo de actuaciones conocedores de la situación que afecta al control de estas fronteras y se hizo con arreglo a

conforme a los principios de congruencia oportunidad y proporcionalidad y a pesar de todo ello

y aunque la iniciativa y aquí se ha hablado de devoluciones en caliente

fue la entrega en frontera y se hizo utilizando un concepto operativo de vigilancia control y rechazo que no ha sido articulado por este gobierno no se utilizó un concepto operativo que se venía utilizando desde antes pero que fue consolidado en el año

es que como es muy peligroso el rechazo en el agua de esos inmigrantes se retrotrae la línea de vigilancia y contención

este concepto de que aunque se llegue a esa línea de agua no se ha entrado en españa ese concepto operativo que no es un concepto geográfico sino un concepto jurídico

anteriores y por lo tanto como digo se basa en que el empleo de la fuerza del rechazo en un medio marítimo supondría un grave peligro para la integridad física de los inmigrantes por lo que les procede a rescatar y a trasladarlos a esa lengua de agua y a partir de ahí a entregarlos

y aplicando lo que dice la ley de extranjería porque la ley de extranjería se aplica cuando se tiene la entrada en territorio español pero como le digo utilizando ese concepto se considera que no se ha tenido entrada en el territorio español y por eso se entregan a las fuerzas marroquíes y por eso

admite a esos inmigrantes los inmigrantes fallecidos lo fueron en aguas marroquíes incluidos los cadáveres que después aparecieron en la parte española y de la autopsia de dichos cadáveres puede deducirse que la causa de la muerte fue el ahogamiento no existe

aunque eso aunque no exista esa causa efecto eso no le quita ni un ápice

pero sí le quita esa causa que todos han enarbolado algunos de forma

de pedir responsabilidades y dimisiones y no se produjo omisión de auxilio

lo que sucedió es que dicha intervención no fue solicitada y las embarcaciones españolas no podían sin dicha solicitud

y en cambio sí se produjo ese auxilio a esos veintitrés inmigrantes que llegaron a la costa ceuta y melilla en este momento son el objetivo prioritario de las mafias que trafican con personas y eso es una realidad

no son sino la trágica expresión y la punta del iceberg de un fenómeno que es mucho más amplio y que es

y aquellos que han tenido responsabilidades de gobierno deberían de tenerlo en cuenta porque la inmigración no es un fenómeno nuevo los flujos migratorios han existido siempre pero ahora en la época de las dificultades económicas

incrementado y tienen un denominador común que es la necesidad y la falta de oportunidades en los lugares de origen y por tanto es evidente que los flujos migratorios se solucionarían si los problemas que afectan a los países de origen se solucionan y en eso estoy de acuerdo con algunos de los que de los que me ha precedido en el uso de la palabra claro que hay que actuar en origen claro que hay que actuar en origen

planteamiento es verdad que no deja de ser una utopía todavía a día de hoy que no se puede dar toda la solución necesaria en origen para que no se produzcan estos efectos y por lo tanto nos hemos convertido en un país receptor de inmigrantes tanto

y todos vemos esas imágenes diarias de inmigrantes ayer mismo hubo más intentando

pero también tenemos que ser conscientes de las obligaciones que tenemos como estado y tenemos que ser conscientes y ser claros en este aspecto qué estamos defendiendo

una política de puertas abiertas o una política de inmigración controlada porque eso hay que decirlo claramente eso hay que decirlo claramente y yo desde aquí quiero poner de manifiesto que tenemos que ser conscientes que la capacidad de acogida es limitada

limitada y españa es la frontera natural de europa en su parte meridional y por lo tanto

europea y por lo tanto se hace necesario que las instituciones comunitarias aborden de forma

migratorios porque este grupo lo dice claramente no es partidario de las puertas abiertas y sí de una inmigración controlada hay otros grupos que también dicen claramente que son favorables a la postura contraria pero hay algunos

y la inmigración de no es un fenómeno que afecta a un solo país y por lo tanto se hace necesario homogeneizar

que tener como principales objetivos como digo una inmigración ordenada así como contener a las mafias que se aprovechan sin escrúpulo alguno

en primer lugar quería agradecer al grupo nacionalistas vascos y al grupo

por esta enmienda transaccional que recoge básicamente las demandas de las organizaciones sociales vascas que se dedican a la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas de lo que trata hoy aquí

alzar la voz en defensa de los derechos humanos estamos hablando de los derechos humanos es absolutamente

impúdico tener que aguantar en esta tribuna que se vulneren

refugiadas que no solo las migratizan sino que además tienen que soportar llegar a lugares ser nuestras vecinas y vecinos y llegar a lugares en los que se encuentran con irresponsables políticos que los criminalizan que hablan de fraudes

mangantes chorizos de guante blanco de traje y corbata que están robando cientos de millónes de euros que lo único que pretenden es

electoral acosta de la disputa entre la propia clase popular

y es la dignidad de estas miles de personas

se dejan la vida y soportan todo lo que tienen que soportar en un mundo avaro y profundamente injusto para tener un futuro mejor para huir de situaciones violentas de situaciones de conflicto y de vulneraciones de derechos humanos que son provocadas

que les obliga a desplazarse les obliga a ser despojados de sus tierras de sus modos de vida y que acaban siendo víctimas

política recordemos que según acnur el sesenta por ciento de las personas que han intentado entrar en el estado español a través de ceuta y melilla provienen de países en guerra como siria malí y república democrática del congo guinea conakry y por tanto son

pero que españa les está impidiendo que se acojan a dicho derecho y no hay más que ver en dos mil trece

cuatro mil personas en el estado español cataluña y euskal herria se acogieron al derecho al asilo

personas se pudieron acoger al derecho al asilo yo me quedo con una frase de un joven superviviente de la tragedia

lo tildaban de agresor

denuncias por parte del ministerio del interior del estado español decía que viajaban

señora llanos en un tono moderado usted ha venido a decir

la exigencia de cumplir la legislación etcétera pero a nosotros nos hubiera gustado que usted hubiera hecho un mínimo de autocrítica de lo que pasó el día seis de febrero

los responsables del gobierno español no dijeron la verdad desde el primer momento los responsables del gobierno español ocultaron hasta varias semanas después hasta dos o tres semanas después no se reconoció que se habían utilizado pelotas de goma en las playas de sí señora el país el día veinte

esto es así y ustedes no hacen la más mínima autocrítica de esto pero es que además de esto

hay que actuar en origen y hay que actuar en la cooperación con estos países y ustedes están haciendo desaparecer

en los presupuestos generales del estado le he dicho antes han reducido el setenta y cinco por ciento de la cooperación que se mantuvo en los gobiernos

no venga aquí a decirnos que la solución está allí y ustedes sigan reduciendo estas ayudas a la cooperación pero es que además ustedes tampoco están invirtiendo en los cetis esos centros

están recortando los recursos para que puedan mantener

ustedes no están ayudando con su política y eso es lo que podrían hacer

ya lo sé que no se puede solucionar todo el problema exclusivamente

pero sí se pueden tomar medidas positivas para que esto se vaya solucionando y ayudar o se puede hacer lo que ustedes hacen que es mirar para otra parte y esperar

que lo que está ocurriendo es un efecto llamada el efecto llamada señora llanos es la miseria que sufren en los países de origen la situación política que se vive en muchos de esos países de origen de las personas que vienen a ceuta y melilla eso es el efecto llamada

a la modificación de la ley le voy a decir simplemente algo que viene hoy mismo en el periódico y dice el secretario de estado de seguridad francisco martínez aseguró ayer en la comisión de interior del congreso que el rechazo de los inmigrantes es legal aunque admitió

yo lo que le pido es que algo de autocrítica en este sentido se haga que usted reconozca que el gobierno español

que el estado español podría hacer mucho más y no lo está haciendo autocrítica señora llanos por lo menos para comenzar y para tener un punto de partida para la solución del problema

esto no se va a solucionar si no hay medidas

de otro tipo no se avanza en la solución del problema insisto comprendo y respeto que la solución global del problema es compleja que requiere de muchísimos actores y de muchísimas actuaciones
pero ustedes primero hagan autocrítica de la política que están llevando en las fronteras de ceuta y melilla y desde ahí podremos empezar a solucionar el problema muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

su papelón de hoy tenía que defender la versión cínica de un gobierno cínico en este caso

aunque se sepa nadar si le están disparando pelotas de goma desde la playa evidentemente es muy difícil nadar contra corriente y contra la acción de la guardia civil que estaba cercana

retrotraerme al seis de febrero porque me parecía que habían pasado diez meses pero usted se ha metido otra vez en ese hay momentos en la historia en los que no se puede hablar de versión hay momentos en la historia en los que hay un hecho y ese hecho

hablamos de quince muertes completamente inútiles y completamente

haber salvado evidentemente no fueron muertes que tuvieran que morir no se podían haber salvado si

intentar que no se acercaran a la playa yo me refería a que desde el seis de febrero la política del gobierno no ha cambiado absolutamente nada es decir yo olvidamos ya el seis de febrero porque hay que avanzar en este mundo pero es que

inútiles y gratuitos no ha hecho que cambie en absoluto la política del ministerio de madrid su ministro sigue

en elevar aún más la altura de las vallas de melilla e intentar comprar más procedimientos electrónicos de visualización nocturna es decir siguen intentando solución militar y la solución policial y en ningún momento se han planteado otro tipo de soluciones esto es lo que nos preocupa que durante los últimos diez meses

el tener quince muertos encima de la mesa le tendría que hacer pensar un poquito

inversiones en material militar y policial pero ninguna solución ni ninguna aplicación de las leyes que le hemos dicho antes la ley de extranjería los dictámenes del defensor del pueblo

y todas las leyes que hay acerca del asilo en la unión europea entonces la crítica va por ahí es decir en diez meses ha habido una inmovilidad

pero es que el origen han sido quince muertos que todavía están frescos fueron en el mes de febrero y su ministro no ha hecho absolutamente nada

gracias de nuevo señora presidenta bien vayamos por partes señor

en mi primera intervención es que lo que se está realizando en ceuta y melilla es que las vallas en ceuta y melilla es que el concepto jurídico que se utiliza

es el que utilizaba el gobierno socialista es que

es que ustedes cuando pasan a la oposición son incapaces de adoptar una actitud responsable y de tener una visión de estado en este asunto le iba a sacar pero creo que es que me voy a remitir a la hemeroteca y si usted se lee las declaraciones del señor alonso

son muy parecidas con relación a la situación de ceuta y melilla con las que el señor fernández hace ahora es que son las mismas

en ningún asunto hacer una política populista una política irresponsable es bueno

en este menos todavía esto sí que es un asunto de

es un asunto de estado en la unión europea y de exigencias por parte de la unión europea y hacer populismo con esta cuestión créame que es muy irresponsable el señor portavoz del pnv dice que no hemos hecho nada y qué quiere que hagamos quitar las vallas si yo se lo he dicho usted si tuviera la política de extranjería si tuviera la competencia de extranjería el gobierno del señor urkullu qué haría puertas abiertas díganlo eso es lo que haría

puertas abiertas claro porque es que se van siempre dicen como no tenemos la competencia pero la discrepancia que tuvo el señor olabarria que es el que trató este tema con el señor fernández

y no mintió señor unzalu no mintió con lo de la utilización no falsee porque se produjo el día seis

y en esa comparecencia en el congreso de los diputados dijo que se habían utilizado medios antidisturbios y se lo he dicho yo en la anterior lo que ocurre usted que dice señor

esa teoría o sea es decir que aquí por ejemplo en nuestra comunidad autónoma

una versión es un poco peligroso eso de que los hechos son los hechos para algunos

los hechos son unos y luego está el atestado de la ertzaintza y lo que dice la ertzaintza y entonces es una versión ya le digo es un poco peligroso

le reitero lo que le he dicho en mi primera intervención se abrieron diligencias en el juzgado de instrucción número seis de ceuta

fueron archivadas y mire

a referir a la dignidad de quien busca un mundo mejor yo se lo he dicho

es verdad la inmigración normalmente se produce por las situaciones que viven en sus países de origen por múltiples causas muchas personas y que van a la búsqueda

tiene el contrapunto de que las capacidades de acogida de los países no son ilimitadas y que por lo tanto se tiene que ordenar la inmigración pero sí le voy a decir una cosa no le voy a consentir

pero es que no me voy a cortar mire yo condeno absolutamente todo y hemos salido

a decir que los mangantes a la calle y los mangantes a la cárcel

cuando usted condene la extorsión política económica y moral más grande que se ha hecho en este país

a los demás una serie de comportamientos mientras tanto lecciones las justas eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaituta